gracias presidenta buenos días a todas y todos señores consejeros señor lehendakari

dos mil nueve el partido socialista de euskadi llegó a un pacto con el partido popular para presentar como candidato a la dirección general de e i te be al señor alberto surio en aquel pacto además de elegir

un nombre específico se explicó perfectamente bien para qué se elegía a esa persona y qué intención había es decir se presentó un nombre y además se planteó un proyecto un contenido y una idea

upyd se sumó a ese acuerdo o se sumó con su voto afirmativo a la elección del señor

de que e i te be dejara de ser una máquina de fabricar nacionalistas lo cierto es que el nuevo equipo

trató de impulsar un cambio pero se encontró con un obstáculo casi imposible de superar yo recuerdo perfectamente bien que a finales del año dos mil nueve

e i te be públicamente dijo lo siguiente e i te be está tomada

y por sectores radicales del partido nacionalista vasco esto es lo que dijo el director de e i te be a finales del año dos mil nueve además

ese cambio que se iba a dar en e i te be fracasó definitivamente y no pudo llevarse

internos con los que se encontró el nuevo equipo

falta de apoyo externo para impulsar esos cambios que nosotros considerábamos absolutamente indispensables a día de hoy lo que tenemos es un acuerdo entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco para que la señora iturbe pueda ser

de e i te be qué es lo que ocurre que en este caso concreto nos plantean un nombre pero no nos dicen para qué no hay contenido detrás no se dice qué proyecto se va a defender qué es lo que se va a hacer

hacia dónde va a ir e i te be a partir del día de hoy de esto no se dice nada únicamente nos plantean un nombre y es una especie de votación a ciegas y por lo tanto nosotros no vamos a entrar en absoluto a votar a favor de esta candidatura

y el partido socialista de euskadi es un acuerdo para repartir o repartirse cargos pero no sabemos el contenido de ese acuerdo y nosotros pensamos

redimensionar profundamente el ente y adecuarlo a los nuevos tiempos ofrecer un servicio público de calidad objetivo y plural y adecuarse a la realidad institucional de la comunidad autónoma del país vasco y que en absoluto sea lo que fue

una máquina de fabricar nacionalistas

la posición definitiva de upyd es el voto negativo porque la candidatura presentada no garantiza nada

a los que se enfrenta e i te be y por eso finalmente upyd votará que no a este acuerdo político en este caso entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco

de radiotelevisión pública entendido como instrumento capital y participación política de los ciudadanos vascos así como medio fundamental de cooperación con nuestro propio sistema educativo y de fomento y difusión

el fomento y desarrollo del euskera todo ello como base y fundamento para el adecuado desenvolvimiento

de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma esto

que mantiene toda su vigencia y que debe seguir consolidándose adaptándose a los nuevos tiempos a las nuevas necesidades y a las nuevas exigencias de los ciudadanos y ciudadanas vascas que son en definitiva los destinatarios de este servicio público

sigue comprometido con estos mismos principios y ese compromiso se plasmará hoy en el voto de confianza a la persona propuesta para dirigir el ente en los próximos cuatro años un voto de confianza que damos también a los profesionales de e i te be

de servicio público profesionalidad y neutralidad informativa promocionando la cultura vasca en los dos idiomas oficiales de la comunidad y haciendo un uso específico y también una tarea específica para la difusión del euskera los socialistas vascos queremos una e i te be

de la convivencia reconocidos en la constitución y en el estatuto de autonomía en defensa del interés general así como los derechos amparados por ambas normas

la convivencia de todos y el respeto al pluralismo político religioso social cultural y lingüístico en este momento en el que corresponde renovar la dirección del ente es bueno recordar literalmente

y por los que debe seguir existiendo la objetividad

la distinción y separación entre información y opinión requiriendo esta última la identificación de quienes lo manifiestan

requerirá la publicidad comercial el respeto al principio de igualdad al pluralismo político religioso social cultural y lingüístico la defensa y promoción de los valores cívicos de la convivencia reconocidos en la constitución y en el estatuto de autonomía en defensa del interés general el respeto al honor la fama de las personas y en particular el derecho

propia imagen el respeto a cuantos derechos reconoce la constitución y el estatuto de autonomía la protección y promoción de la juventud y la infancia

estableciendo a efectos de la utilización del euskera los principios básicos de programación

televisivas en lengua vasca en la comunidad autónoma vasca estos y no otras

igual que estas y no otras fueron las bases sobre las que dimos nuestra confianza

en los últimos cuatro años y la dedicación a este servicio público esta cámara se ha tenido que pronunciar en varias ocasiones en defensa expresa de la libertad de expresión que ha sufrido más que la amenaza totalitaria

ganada día a día por numerosos profesionales de la información que superaron el miedo para hacer valer el derecho de los ciudadanos a recibir información plural

a todos los profesionales de la información en un momento en que esta pluralidad

y por la progresiva precarización de sus condiciones laborales así lo hemos expresado en este parlamento

que se está produciendo en el sector que provoca una eliminación de oportunidades de expresión y de opinión en este contexto el servicio público de radiotelevisión debe ser la garantía

y en este contexto de profunda crisis y reducción general de recursos públicos e i te be debe seguir abordando el redimensionamiento de sus estructuras para adecuar a la nueva situación

este es el difícil reto que empezó a asumir el anterior equipo dirigido por alberto surio

legebiltzarkideok egun on guztioi haber cosechado un sonoro suspenso en la gestión de e i te be haber impulsado en e i te be unos servicios informativos profundamente tendenciosos y que no responden a lo que son los criterios de una radiotelevisión pública

a una situación de constante deterioro y debilitamiento hauek eta honelakoak entzun izan ditugu azken urteetan eaj ren ahotik

se sustanció en este pleno la interpelación presentada por este grupo relativa a las acciones a realizar por el gobierno en relación al buen trato a las personas mayores y a las políticas a llevar a cabo en la prevención y en la dedicación de conductas de maltrato

como dije en ese momento y quiero reiterar hoy aquí dado la importancia de los datos en este tema el porcentaje de personas mayores está aumentando

años que en el resto y lo está haciendo igual que en el resto de europa y de españa también en euskadi y aquí aún más si cabe porque como dije

dos puntos por encima de la media de españa y además en el año dos mil veinte representará el veinticinco por ciento y también

es superior es una de las más elevadas de la unión europea siendo como dije entonces de ochenta y cinco coma siete años en las mujeres y setenta y nueve

de la salud y la capacidad funcional de las personas mayores pero también políticas dirigidas al incremento de su participación social y de su seguridad hay que conseguir

y a elaborar el segundo plan de acción internacional sobre envejecimiento

las conductas de vulneraciones de derechos que como aquí se dijo entonces no se vulnerarían en otros grupos de población sin embargo

mientras que en el ámbito de la violencia contra las mujeres se empieza a avanzar notablemente incluso en el ámbito del maltrato a menores en cambio en el ámbito del maltrato contra las personas mayores este permanece todavía en gran medida oculto hay muchos estudios que ponen de manifiesto que esta ocultación hace que

en muchas ocasiones porque las personas mayores no son conscientes de estas conductas de malos tratos y en otras ocasiones porque aunque lo sean no quieren denunciar

preocupante que el maltrato existe también en las personas mayores

en un entorno comunitario doméstico en cuidados de larga duración en la sociedad en general etcétera

fue elaborado por el anterior equipo del gobierno vasco se establecía

malos tratos sospecha percibida por la propia persona mayor y además los entrevistadores sin que esas personas lo percibiesen sin que esos entrevistados lo declarasen también cifraron que había en ocho mil doscientos ochenta casos más conductas de maltrato es decir que

supuestos de sospechas de malos tratos a personas mayores además

lo que lleva a pensar la consistencia de esos datos dentro del tipo de malos tratos percibidos en euskadi en el informe señala que en primer lugar nos encontramos con los malos tratos psicológicos seguidos de la negligencia y por último de los malos tratos físicos y sexuales

por una parte evidenciar que es necesaria una mayor protección y poner en marcha los mecanismos pertinentes

por otra nos permite disponer de una aproximación cuantitativa a la realidad que tiene gran importancia para poder abordar después acciones que acaben con este tipo de situaciones

moción que se traiga a esta cámara creemos que es verdad que es necesario partir de los datos del estudio mencionado pero quizás el departamento debiera plantearse ir más allá de la sospecha

una investigación más exhaustiva y profunda que permita disponer de datos consistentes permita disponer de datos confirmados de la situación real de los malos tratos en euskadi

hacerse en las residencias y en los centros de día porque las diputaciones denegaron esta

una vez obtenidos esos datos hay que abordar la planificación de las acciones de sensibilización y concienciación para evitar no solo conductas de malos tratos a personas mayores

llevar a cabo un cambio de actitud hacia el envejecimiento con una mayor exigencia social hacia el trato que se dispensa a los mayores es cierto que en la anterior legislatura se elaboró un documento

bases para un plan de acción en el propio título del documento así lo establecía lo que se recogía en ese documento eran las bases para un plan de acción

de la interpelación presentada se puso de manifiesto que se iban a abordar acciones por parte de este gobierno por parte

políticas en este sentido pero estimamos necesario que todas estas acciones por su importancia

o de cualquier o denomínese así o de cualquier otra forma

debatir y hacer aportaciones por parte de todos los grupos un plan que se trabaje y que se coordine en colaboración con otras instituciones y agentes sociales en este plan se debería partir del documento anterior evidentemente y debería de tener distintos apartados y acciones en primer lugar deberían de estar las acciones de sensibilización

pero deben seguir realizándose es preciso crear una conciencia social de la existencia del maltrato y el abuso a personas mayores

concienciar que la existencia de malas prácticas y de situaciones de abuso de confianza dentro de los ámbitos familiar institucional y social y así mismo es necesario

hacia el mantenimiento de su dignidad una concienciación de que las personas mayores siguen jugando por derecho un papel relevante en nuestra sociedad en un segundo bloque de este plan debería estar el diseño y puesta en marcha de acciones de formación

un paquete de intervenciones programas específicos que permitan la detección

del maltrato a personas mayores en todos los ámbitos familiar institucional y social intervenciones que algunas pudieran ser las ya establecidas en ese documento base o bien las incorporadas procedentes de propuestas de los grupos de otras instituciones de agentes sociales o de experiencias llevadas a cabo

también creemos que es necesario la elaboración de un protocolo un protocolo que permita coordinar y unificar criterios y actuaciones a la hora de que los profesionales que puedan estar en situación de detectar los posibles casos de malos tratos

con rapidez para prevenir y denunciar estos casos en esta línea el anterior departamento puso en marcha un teléfono gratuito para que las personas mayores posibles víctimas de malos tratos

este teléfono se nos dijo por parte del consejero que probablemente no se fuese a mantener dado el escaso éxito del mismo en otras comunidades autónomas como por ejemplo

este grupo considera que quizás antes de su supresión debiera llevarse a cabo un análisis del porqué

actuando de otra manera dicho teléfono pudiera tener más éxito como he dicho un conjunto de medidas que

para que entre todos los grupos y con la participación de otras instituciones y de los agentes sociales llevemos a cabo un documento que se debata en esta cámara y a partir de ahí

acciones nuevas por eso desde aquí solicito su apoyo para esta iniciativa

para que todos los grupos podamos hacer aportaciones para que entre todos podamos conocer

y para que entre todos podamos diseñar acciones dirigidas

este tipo de conductas y a desarrollar políticas de buen trato a personas mayores
sin más les pido el voto favorable a esta iniciativa nada más muchas gracias eskerrik asko

lehendakari señorías egun on denoi debatimos hoy aquí sobre las actuaciones dirigidas

de malos tratos recordar en primer lugar que son varias las ocasiones que en este parlamento se ha hablado sobre los malos tratos a las personas mayores

el parlamento vasco solicitó al gobierno vasco mediante una proposición no de ley la elaboración de un estudio sobre la problemática del maltrato a las personas mayores

y en base a las conclusiones de ese estudio se articularían planes protocolos e intervenciones más adecuadas así como las pertinentes campañas de sensibilización

y su entorno que eviten la vulneración de sus derechos esta proposición no de ley aprobada por unanimidad en la cámara y en cumplimiento a este mandato

campañas de prevención de maltrato a las personas mayores y como ha dicho la señora llanos un teléfono de atención y denuncia de situación del maltrato

servicios y es cierto que según las palabras pronunciadas por el consejero el señor aburto en el pleno de control del pasado veintidós de febrero

ejecutivo continuar con el teléfono de atención y denuncia del maltrato a personas mayores y a este respecto he de apuntar que no se debe pasar por alto

necesitan una continuidad en el tiempo y complementariedad con otras intervenciones en el ámbito de la prevención de los malos tratos y adquisición de competencias

se aprobó por unanimidad otra proposición no de ley en la que instaba al gobierno vasco

de la comunidad autónoma de euskadi y así en cumplimiento

compareció en la comisión de empleo y políticas sociales el trece de septiembre de dos mil diez

de las personas mayores en euskadi que permitió conocer en profundidad los elementos diferenciales que determinaban los distintos grados y características de las necesidades sentidas

en situación para dar las mejores y más adecuadas respuestas a sus necesidades seis meses más tarde el once de febrero de dos mil once en la misma comisión la señora zabaleta presentó el informe de prevalencia de malos tratos a personas mayores un estudio

aproximación orientativa a la realidad de los malos tratos en las personas mayores y cuyos datos

para la elaboración de un plan de acción para las personas mayores contando con la participación de las diputaciones de los ayuntamientos y del consejo de mayores

una importante línea de actuación contra los malos tratos que supone la realización de medidas de sensibilización y conciencia social iniciativas

así como acciones de formación de los profesionales y de las personas cuidadoras en el ámbito familiar así como trabajar en programas de prevención e intervención el grupo socialista considera que debemos seguir trabajando en la prevención

y atención a las personas mayores que sufren malos tratos con la puesta en marcha de mecanismos adecuados

por supuesto medidas de protección a un colectivo tan vulnerable en base a lo expuesto anteriormente el grupo socialista presentó una enmienda a la totalidad

a las personas que envejecen que elaboró el gobierno socialista y a elaborar un protocolo de actuación para la detección de malos tratos para con las personas mayores con diputaciones forales y ayuntamientos finalmente hemos firmado una enmienda de transacción con el grupo nacionalista que recoge en su primer punto que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a desarrollar y evaluar de forma continua

el plan de acción para avanzar en el bienestar y el buen trato de las personas que envejecen que elaboró el anterior gobierno teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados en la comisión permanente sectorial de personas mayores del consejo vasco de los servicios sociales

insta al gobierno vasco a elaborar un protocolo de actuación para la prevención y atención a las personas mayores que sufren malos tratos en colaboración con las diputaciones forales y ayuntamientos no entendemos por qué la señora llanos no ha querido firmar esta transacción porque

zenbat kasu zehatz dauden jakitea gehienak susmoak baitira la mayoría de los datos que tenemos se basan en sospechas como usted ha vuelto a recalcar hoy señora llanos porque las personas mayores no denuncian

normalmente de su entorno más próximo y de los que dependen para muchas de sus actividades cotidianas o bien porque ni tan siquiera son conscientes de ser sometidos a malos tratos

existen varias formas de malos tratos físicos psicológicos económicos importante dato a tener en cuenta ante la grave situación económica que padecemos abandono desamparo además es importante traer a colación como otro tipo más de maltratos a mayores el trato indigno que reciben a veces

señora llanos ha hecho referencia no entendemos por qué el partido popular se empeña en realizar un nuevo plan estratégico respecto a las medidas contra el

y el de buen trato a las personas que envejecen cuando existen estudios recientes que debidamente desarrollados consiguen el objetivo pretendido por el partido popular que no es otro que

como ya se explicó en la interpelación existen dos estudios sobre esta materia uno realizado en la pasada legislatura denominado cien propuestas para avanzar en el bienestar y el buen trato a las personas que envejecen bases para un plan de acción que sirvió

este estudio incluía campañas de sensibilización que nos parecen fundamentales para dar a conocer esta realidad a la sociedad en general aunque se ha constatado tal y como

el viernes pasado que no llegó lo suficiente al colectivo que está sufriendo directamente la situación de maltrato o trato indigno en este mismo sentido además de la elaboración y difusión de folletos y manuales sobre los malos tratos es imprescindible la formulación de una guía

a los y las profesionales del ámbito sanitario y del ámbito social para que pongan en marcha los mecanismos en el mismo establecidos ante la más mínima sospecha de maltrato a mayores además

mediante los cuales están desarrollando políticas de formación en buen trato y prevención de malos tratos a personas mayores a través de los programas etxean ondo y el programa acompaña

el ámbito en el que se producen los malos tratos normalmente el entorno familiar

por lo que nos parecen muy importantes algunas iniciativas que están llevando a cabo las diputaciones forales destinadas a visitar y conocer la realidad de esas personas para saber si realmente quienes las acompañan ejercen adecuadamente

por lo tanto aprovechemos los trabajos existentes y desarrollémoslos para mejorar la prevención detección y atención de las personas mayores que sufren malos tratos

a realizar planes que ya existen azaldu dugun guztiagatik aurkeztutako osoko zuzenketak

estamos de acuerdo en la importancia de este tema en la necesidad de concienciación y sensibilización pero creemos que ya existen estudios y planes y lo que ahora corresponde es desarrollarlos y por eso pedimos el apoyo de la cámara a la enmienda transaccional firmada
entre euzko abertzaleak y el grupo socialista eskerrik asko eskerrik asko

de acuerdo con la propuesta planteada por el grupo popular por la señora llanos sobre un asunto que pasa bastante desapercibido en la sociedad pero que

ciertamente preocupante en definitiva un asunto quizás poco mediático pero como digo de enorme importancia esta sociedad ha avanzado mucho en la

y especialmente en el campo de los malos tratos hacia las mujeres pero queda mucho por avanzar en el campo del maltrato infantil y en el maltrato a las personas mayores

es complicado detectarlos porque prácticamente no hay denuncias como aquí se ha planteado las víctimas son personas muy vulnerables y dependientes y en la mayoría de los casos

familiar personas de las que dependen para gran parte de su actividad vital por lo que es complicado que den el paso de hacerlo público de denunciarlo vergüenza

hacen que estemos en cifras de denuncias simbólicas además muchas veces ese maltrato se trata de abandono

situaciones de muy difícil detección y difíciles de demostrar salvo en sus casos más extremos es por ello que nos parece muy importante que se dote de las herramientas necesarias para poder detectar los malos tratos en todos sus aspectos psicológicos físicos sexuales económicos

especialmente los profesionales que están más cercanos a nuestros mayores los sanitarios y los trabajadores sociales es decir el gobierno tiene que trabajar con el resto de instituciones con los ayuntamientos y las diputaciones y con osakidetza para avanzar en este campo

un plan integral que contemple medidas contra los malos tratos a las personas mayores y apoyaremos por lo tanto la moción planteada si esta moción no sale aprobada

transaccional firmada entre el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialistas vascos nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkariak dauka

por cuidar a mi aita o a mi ama me tienen que pagar cuando entiendo que debe de ser una obligación que tiene que ver con la responsabilidad

señora presidenta y por hacer simplemente un par de matizaciones porque yo creo que en este tema hemos hablado mucho y vamos a tener ocasión de seguir

las posturas están bastante claras con relación al nuevo plan no es que sea un empecinamiento de este grupo

que sí es necesario y en ese plan yo hacía referencia en mí primera intervención a la necesidad partiendo de la importancia del estudio anterior que

y lo reconocemos hoy aquí porque significa una aproximación a la existencia de un importante número de sospechas de

los dos tipos pero como he dicho también antes es un estudio por una parte incompleto porque no dicho por esta parlamentaria sino por la propia consejera cuando lo presentó no se pudo llevar a cabo una investigación en el ámbito residencial

porque las diputaciones forales no quisieron colaborar en el mismo luego por una parte no da una dimensión completa ni si quieres de la sospecha pero también consideramos

quizás fuese necesario plantearse el llevar a cabo un estudio

yo misma he reconocido en mi primera intervención de la dificultad de llevar a cabo ese estudio y de conocer la situación real de los casos de malos tratos y también he expuesto las razones pero creo que es importante que tengamos

lo ha solicitado que se haga a nivel nacional en el conjunto de toda españa porque creemos que es importante es importante por una parte para ver cuál es la tipología de malos tratos que más existe con datos reales y también para ver en qué ámbitos

a saber cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo y con relación al plan de acción nosotros también hemos reconocido la importancia

en su exposición cronológica que ha hecho

ha puesto de manifiesto que ese plan no ha venido a este parlamento ni siquiera ha sido presentado en este parlamento sí en el ámbito del consejo de personas mayores sí

parlamento y si se va a la web del propio gobierno vasco este documento no aparece como plan sino va lo que ves esto que es lo que yo he dicho bases para un plan de acción pero dentro del conjunto de planes de los que dispone el gobierno vasco no está este plan no es considerado este documento como un plan y es más

cuando la consejera presentó el estudio sobre las condiciones de vida de los mayores

aquí decía que se iba a llevar a cabo un plan de acción para las personas mayores dos mil once dos mil quince que finalmente no se llevó a cabo

que es un documento muy importante que es un documento en el que hay que trabajar y por eso creo que los esfuerzos a realizar ese documento que además fue elaborado por la fundación matia que no es un documento

creo que no sería la disposición de recursos que habría que hacer no sería tan elevada puesto que mucho del trabajo está ya hecho por el anterior departamento pero

nosotros no hemos entrado a firmar la enmienda aunque es cierto que más vale

nosotros si no se aprueba nuestra iniciativa apoyaremos la enmienda transaccional porque evidentemente estamos a favor de que se sigan desarrollando estas acciones y que desde luego se tenga en cuenta la opinión de las personas mayores pero nosotros seguimos considerando necesario no hemos puesto pusimos un plazo de un año durante todo este dos mil trece pero consideramos que si fuera necesario más plazo yo así lo hablé con alguna de

no tendríamos ninguna pega en dar más tiempo para elaboración de este documento pero sí consideramos

para que todos podamos realizar aportaciones nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak taldearen

señora llanos efectivamente hay un estudio que evidencia

mayores nada más y nada menos que aparecen se estima que de entre la población de personas mayores en la comunidad autónoma vasca de más de sesenta años que son quinientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y ocho personas

malos tratos es un dato obvio y evidente como para pensar que el maltrato a las personas mayores en particular y el maltrato en general es una preocupación compartida por todos los grupos de esta cámara

debe ser el conseguir que las personas mayores sean valoradas y no sean limitadas a través del maltrato y esto se alcanza efectivamente con políticas

y proporcionando por supuesto ayudas a aquellos que lo sufren y previniendo la ocurrencia de los mismos y por supuesto que todas las instituciones y poderes públicos debemos empeñarnos

desarrollo de una ley que es muy importante para nosotros que es la ley de la promoción

de dependencia y eso también hay que hacerlo en el marco abierto que nos brinda el desarrollo de la ley de los servicios sociales

diputaciones y ayuntamientos y como no podía ser de otra manera que contempla un compromiso claro con la atención a las

que son las diputaciones forales y los ayuntamientos quienes tienen una mayor capacidad para detectar los malos tratos a las personas mayores y para actuar sobre este tipo de situaciones

ese campo señora llanos nosotros en la enmienda transaccional que hemos firmado con el grupo eaj le voy a leer su primer apartado nosotros instamos al gobierno vasco a desarrollar y evaluar de forma continua en el marco de sus competencias ese plan de acción

con estudio con la presentación de ese estudio y bueno con todas las acciones que llevó anteriormente el ejecutivo vasco del gobierno socialista y que creo que no se puede quedar en aguas de borrajas y que tiene que continuar el ejecutivo del gobierno nacionalista

además nosotros entendemos que hay que respetar los acuerdos alcanzados en la comisión permanente sectorial de las personas mayores del consejo vasco de los servicios sociales y además añadimos en el segundo apartado que instamos al gobierno vasco a elaborar un protocolo de actuación para la prevención detección y atención a las personas mayores

en colaboración con instituciones que en este momento creemos que son super importantes en esta materia como son las diputaciones forales y ayuntamientos entonces

y nosotros creemos que hay que pasar ya a lo que se llama acción eskerrik asko eskerrik asko sarasua andrea jarraian euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

reconociendo la importancia del plan que además ha reconocido que le da igual que sea plan estudio o documento pues bueno

dice la enmienda transaccional con esa evaluación de forma continua y en el caso de que se vea que no es suficiente que hay aspectos que no

por dicho plan por dicho estudio será el momento de entre todos mejorarlo pero vamos a darle una oportunidad vamos a aprovechar

económicos sino de todo tipo de recursos vamos a aprovechar lo que hay desarrollémoslo evaluémoslo y en la medida que vayamos evaluando y si vemos que hay

a darle una oportunidad es cierto también

en la enmienda transaccional que se haga un protocolo para detectar cuanto antes y ahí se habla de que se haga junto a las diputaciones

son los que tienen relación directa con las personas que pueden estar sufriendo malos tratos por lo tanto ya estamos también intentando

y los ayuntamientos participen de ese protocolo beraz bakarrik poztu egiten garela ematen duelako aho batez

gracias presidenta lo cierto es que la fundación onkologikoa ha conseguido

como un referente en la investigación prevención diagnóstico y tratamiento del cáncer por eso creo que

comenzar esta intervención haciendo un reconocimiento expreso al gran trabajo realizado hasta ahora por parte de la fundación y en concreto al trabajo

un centro puntero en un campo tan complicado difícil y sacrificado como es el relacionado con la oncología upyd

y defiende como principio incuestionable una sanidad pública universal y de calidad eso no quiere decir que estemos en contra

de calidad y que efectivamente en eso deberíamos centrarnos y centrar

por eso nos parece que un centro como el oncológico de san sebastián puede y debe ser completamente público a estas alturas no tiene mucho sentido

esté pagando alrededor del ochenta y cinco por ciento del total del presupuesto

del centro nos parece que es un lujo y en cierta medida un derroche que en san sebastián onkologikoa y que en el hospital donostia a solo unos metros de distancia

en este campo a nuestro juicio sería mucho más lógico que todos los equipos relacionados con la oncología estuvieran centralizados en un solo centro se aprovecharían en nuestra opinión mucho más los recursos técnicos las sinergias de trabajo lo equipos profesionales o las investigaciones y eso sería posible si osakidetza se hiciera cargo completamente

ciertamente punteras el consejero de sanidad ha rechazado integrar onkologikoa en la red pública y sin embargo ha abogado por firmar un concierto

del centro no nos parece la situación adecuada y no despeja las dudas para los próximos años porque todo dependerá

lo cual si en un momento determinado no lo considera adecuado podría optar por venderlo a una organización sanitaria privada por ejemplo en nuestra enmienda nosotros lo que pedimos

se ponga ya a negociar con la obra social de la kutxa la integración de onkologikoa en la red pública pensamos que no debería ver demasiados problemas para ello

en el segundo punto que venga dentro de tres meses a este parlamento a darnos cuenta de cómo van esas negociaciones y finalmente le pedimos a kutxa y a osakidetza que mantengan la financiación necesaria para que onkologikoa siga funcionando con completa normalidad

que el consejero empiece ya a negociar la integración en la red pública que antes del verano nos cuente cómo va el proceso y mientras tanto se mantenga el apoyo de osakidetza

en nuestra opinión por lo tanto el oncológico debe tener un carácter público y la mejor forma de garantizarlo es su integración completa

tal y como planteamos en nuestra enmienda de totalidad que hemos presentado nada más y muchas gracias eskerrik asko

aunque coincida en parte con las intervenciones de mis antecesores en el uso de la palabra

una visión un poco más particular nuestra y que creo que será

el instituto oncológico de san sebastián desde su origen ha estado vinculado al ahorro de los guipuzcoanos y de

la diputación de gipuzkoa y el ayuntamiento de san sebastián fueron quienes contribuyeron a la construcción y puesta en marcha del primer edificio del entonces denominado instituto anticanceroso que se inauguró en mil novecientos treinta y tres desde el origen también

en un principio privadamente pero también a través del concierto con la seguridad social desde muy tempranamente puesto que el primer concierto

desde entonces sin interrupción ha venido manteniendo conciertos para poder seguir ofreciendo sus servicios a toda la sociedad sin distinciones

renovó con el entonces instituto de la seguridad social para la gestión de la salud

desde mil novecientos ochenta y ocho a pesar de esta estrecha relación con los gestores públicos de los servicios sanitarios la planificación y desarrollo del centro ajena a las necesidades de la sanidad pública siendo su colaboración complementaria siempre pero nunca ha participado en la planificación sanitaria que desde

se hace para ofrecer y gestionar los servicios sanitarios a la población pudiendo haberse dado situaciones de duplicidad descoordinación etcétera a pesar

de que aproximadamente el ochenta y cinco por ciento de su trabajo y financiación se realiza

la concertación es garantía de futuro pues no lo creemos así primero motivado por la privatización de la propia kutxa o ya

que garantizaba con su obra social una financiación estable

en inversiones como en su mantenimiento y debido al presupuesto menguante que tiene ya la actual

ha crecido una gran preocupación entre los ciudadanos y entre los trabajadores del centro respecto a su futuro porque se da la posibilidad de que el centro pudiera terminar vendido a una empresa privada lo que sería

injusta del patrimonio de todos los guipuzcoanos y sus instituciones quienes durante tantos años han contribuido con su ahorro y sus impuestos

mediante un convenio entre ambas partes para que durante un periodo transitorio necesario por un lado para acercar las culturas de ambas organizaciones kutxa a través de su obra social continúe financiando el oncológico al menos con la misma cuantía con la que lo viene haciendo

creemos que con esta decisión ganan todos ganan los guipuzcoanos que continúan recibiendo los servicios sanitarios del oncológico con total accesibilidad equidad calidad y gratuidad ganan los trabajadores que en esta época de tanta incertidumbre tendrían la esperanza de un futuro estable y de calidad gana kutxabank

podría una vez finalizado el periodo transitorio dedicar sus esfuerzos es verdad que menguantes de obras social a otras áreas también muy necesarias y gana la sanidad pública que financiando el centro en un ochenta y cinco por ciento hasta la fecha no ha podido tomar ninguna decisión acerca de la planificación de los servicios oncológicos que presta el propio oncológico teniendo en cuenta

debería de tener en cuenta todos los servicios oncológicos que existen en la provincia

podría ofrecer unos servicios unificados más fuertes más eficaces evitando duplicidades y competencias innecesarias

es absolutamente obligatorio en la situación crítica actual

de hecho lo ha puesto en práctica con anterioridad tanto en el área de educación les recuerdo a ustedes la incorporación de las ikastolas a la red pública siendo consejero

tenemos dos buenos y exitosos antecedentes uno de ellos en el mismo territorio de gipuzkoa el hospital del alto deba que nació como propiedad privada de las cooperativas

en mil novecientos ochenta y siete y el otro ejemplo es el hospital basurto

con donaciones de benefactores privados tuvo una larga vida como hospital privado es verdad que con vocación pública hasta que en mil novecientos noventa y dos se integró de manera completa en la red pública

hospitales universitarios de osakidetza por tanto la enmienda que planteamos

no es ninguna rareza garantiza la estabilidad de un centro muy importante para el territorio histórico de gipuzkoa y facilita una planificación

más eficiente y más sostenible de todos los servicios sanitarios que existen

analicen con mucho interés la enmienda que hemos presentado y si no concita la unanimidad espero que por lo menos la mayoría muchas gracias eskerrik asko

señorías bueno es de agradecer que el partido socialista que bildu y que

el problema al que nos enfrentamos es que los festivales suelen estar bien y las demagogias pueden ser aceptables cuando no afectan y cuando no tratan

voy a también ahorrarles un desarrollo histórico de lo que ha supuesto

otros antes que yo lo han hecho pero desde que la reina maría cristina lo presidiera presidiera la liga

y desde que pasara a denominarse instituto alfonso trece

pocos años después es cierto y este dato es importantísimo a nuestro juicio

cuando el instituto oncológico pasa a formar parte como obra social propia de la entonces caja de ahorros provincial y este es un dato

mil novecientos cincuenta y dos y en ese sentido lo que también

las intervenciones de los tres grupos mencionados es poner en valor porque nos parece justo poner en valor

los profesionales los trabajadores y los gestores

de san sebastián y también poner en valor la labor que han hecho están haciendo y seguro

la kutxa a través de su obra social por encima de demagogias y por encima alarmistas y catastrofistas es importante que en este país nos empecemos a creer que también los privados lo hacen muy bien no solo ustedes los que se consideran políticos exentos de cualquier error o falla en ese sentido hay que también reconocer y recordar

y es que hoy el oncológico es una realidad gracias al papel desarrollado por la kutxa

por la kutxa quien tiene repito quien tiene encuadrado este servicio dentro de su obra social propia y la última gran intervención que se ha pasado por encima por parte de algunos portavoces así como una cosa menor

que se inauguró después de dos años y medio se inauguró en el año dos mil nueve

más de sesenta millónes de euros con cargo a los presupuestos de la obra social de kutxa creo que conviene también recordarlo aunque para algunos sea una cuestión menor

y que en el año dos mil diez kutxa introduciendo elementos de gestión más eficaz de común acuerdo con la sociedad guipuzcoana podíamos decir y con las instituciones vascas

decide dotar de una nueva estructura organizativa a onkologikoa

que le permita responder mejor a los retos presentes y futuros y que además le dote de una estructura organizativa más sólida y crea

privada creo que es importante repetirlo es una fundación de carácter privado sin ánimo de lucro sin ánimo de lucro lo cual viene a demostrar y a desmontar también alguno de los argumentos establecidos aquí

materialmente imposible privatizar algo que ya es privado es decir sería extraño que o por lo menos la cuadratura del círculo que los gestores

quisieran privatizar lo que ya es de naturaleza privada qué está sucediendo por hablar con claridad qué está sucediendo y es que la difícil situación económica por la que atravesamos está generando incertidumbres y está generando miedos es lógico porque si solo fuera onkologikoa pero díganme ustedes en la sociedad actual

quién no tiene incertidumbres y quién no tiene miedos en el contexto económico en el que nos desarrollamos y con lo cual hasta ahí hasta ese punto son lógicos insisto esos miedos

que el ochenta y seis por ciento de los ingresos de los recursos con los que cuenta el onkologikoa ochenta y seis ochenta y siete por ciento provienen vía convenio de

y dadas las circunstancias presupuestarias dadas las circunstancias de ingresos de las administraciones públicas que ha ustedes algo le suenan

en este parlamento hace bien poco es normal que quienes gestionan

desde la responsabilidad de gestores quieran tomar decisiones para prevenir o para actuar insisto en unas circunstancias económicas adversas y complicadas

actúo e intento garantizar con mi actuación y con mi gestión que el servicio que presto sigue siendo de calidad universal

y eficaz y la realidad es que si no metemos demasiado la mano en cosas que están funcionando si los políticos no volvemos a entorpecer la gestión de aquellos que hacen bien su trabajo el instituto oncológico puede llegar a convertirse en mucho más de lo que es ya puede llegar a convertirse también en un referente en la materia

europa y para ello lo que están haciendo los gestores y lo que debemos empujar entre todos es ofrecer más servicios oncológicos

algo fundamental en el mundo que nos viene y en el mundo actual de la sanidad y es fortalecer la investigación propia

propios lo que además también va a provocar nuevos ingresos tremendo y lo que hacen los gestores

para ofrecer nuevos servicios y además intentar obtener

más ingresos insisto tremendo verdad claro estamos ante un proyecto una infraestructura una institución que funciona una infraestructura un servicio que está bien gestionado aunque ustedes no lo hayan repetido o no les haya interesado mucho decirlo pero alguien se pone nervioso

y monta un argumento político que está basado en la nada en suposiciones en miedos

en proyectar sombra de sospechas sobre el futuro de una institución que está bien gestionada y que funciona

complicado y con unos gestores que quieren hacerlo mejor que quieren abrir nuevos mercados

más ingresos y claro de repente tenemos esta demagogia bolivariana que empieza por la señora ubera

están ustedes jugando con la salud del pueblo nada más y nada menos en esta tribuna hace pocos minutos

están jugando ustedes con la salud del pueblo y dice usted también

semejantes frases gruesas que no se concretan en nada

que nos lleva a la nada que nos lleva al desprestigio

en euskadi y que si estuvieran en manos de otros desde luego funcionarían infinitamente peor

señor consejero es doble dejemos trabajar a los que saben y a los que lo están haciendo con éxito hasta la fecha y confiemos en que si lo han hecho hasta la fecha con éxito lo van a seguir haciendo

y que colabore osakidetza como lo ha venido haciendo con éxito y con eficacia y que se renueve el convenio para que este modelo siga siendo un éxito porque luego también se suma al festival bolivariano upyd y nos dice

plenamente público no puede ser el concierto lo adecuado y también tan ancho esas frases tan genéricas que de no concretarse pues eso demostrará la demagogia bolivariana

podría querer venderlo y estamos con los condicionales y con estas suposiciones podría oiga yo suelto aquí empiezo

digo que viene no sé quién que lo va a privatizar y que nos vamos a morir todos

se decide privatizar oncológico y la señora roncal

que por cierto me pregunto yo señora roncal qué pensaría el asesor de obama si le llega a usted oír decir lo que ha dicho hoy aquí porque

sobre este equipamiento sobre este servicio pero es que ni por asomo y claro

y es se da la posibilidad podría ser que alguien quisiera en algún momento determinado por lo tanto vamos aquí a darle

y a ver qué pasa verdad pues bien ustedes lo que quieren y me parece muy legítimo pero no menos legítimo quienes nos oponemos a ese modelo es engordar a cualquier costa la cosa pública hasta que explote

hasta que todo caiga y se desmorone pero es que no lo pagan ustedes es que lo pagan los ciudadanos con sus impuestos y es que la demagogia está muy bien pero cuando uno se la costea

ustedes la izquierda bolivariana vasca el triunvirato lo que quieren es que todos paguemos con nuestros impuestos sus demagogias
semper jauna amaitzen joan mesedez y voy terminando termino ya el mundo

y es el de la colaboración público privada y es el de aprovechar las sinergias y es el de aprovechar las capacidades de los que saben de los profesionales que gestionan con eficacia y a los poderes públicos nos corresponde empujar ayudar y garantizar

universal y de calidad y eso hoy se garantiza

metemos la pata va a seguir estando garantizado muchas gracias eskerrik asko semper jauna erantzuteko txandan ubera aranzeta andreak dauka hitza

los últimos datos aportados de utilización actual del oncológico nos ratifican aún más

ni para hoy ni para el futuro por tanto hay que dar un paso más y que la integración plena exige la incorporación a la sanidad pública los argumentos se han dado

las gracias al señor portavoz del pp

ya que su intervención ha sido el mejor ejemplo de colaboración nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo

onkologikoa está concertado establemente con el departamento de salud y que está integrado funcionalmente en el sistema sanitario vasco para aquellos aspectos suscritos en el convenio

el responsable de la orientación gestión y planificación del oncológico es la propia fundación

gestionar el sistema sanitario de euskadi y enese cometido

onkologikoak no consulta al departamento de salud onkologikoak erabakitzen du bere teknologia

preguntaba entiendo que retóricamente la señora ubera que no sé a qué viene tanto nerviosismo y me miraba

la sorpresa o la incredulidad ante determinadas manifestaciones usted decía

y los juegos de palabras seguidamente dice ustedes están poniendo la alfombra roja a la privatización y a su cierre

a la privatización y a su cierre del oncológico y seguidamente dice no es nuestra intención crear alarmismo vuelvo al principio de su intervención no sé a qué viene tanto nerviosismo dejar la dialéctica y los juegos de palabras o sea el festival de lo que ya les he dicho antes no sé si les ha gustado o no y dice también los datos objetivos son muy crudos oiga datos objetivos usted no ha aportado aquí ninguno

al menos uno ya que hay tantos y son tan crudos uno y la señora

del acuerdo y del entendimiento entre partidos políticos que también que eso está muy bien más haya de esta cámara hay un mundo apasionante más haya del juego de los políticos hay un mundo por descubrir y fuera

fuera los particulares los privados los profesionales se empeñan en buscar nuevas vías de financiación cómo poder sacar adelante proyectos complejos que hoy día

mucho más reducidas de lo que pasaba hace veinte años es decir el mundo se mueve

también los privados quieren que la sociedad funcioné y que esto vaya bien eso está pasando fuera

lo menos que podemos hacer es ayudar y es empujar y es colaborar y que esa colaboración y por ahí va el futuro a nuestro juicio el futuro de la sociedad y para acabar

una estrategia de privatización por parte de kutxa a la hora de

es decir derivar pacientes de una entidad privada a la pública para darle importancia al oncológico seguro

la pregunta y con esto acabo esta sí que es una pregunta retórica señora ubera

no será que ustedes son demasiado rehenes de sus prejuicios no será eso muchas gracias señora presidenta eskerrik asko semper jauna

sí sí gracias presidenta únicamente para decir que obviamente daremos el apoyo a esta iniciativa gracias eskerrik asko maneiro jauna

señora presidenta desde el escaño también para decir que en coherencia con

sobre esta cuestión en la legislatura anterior también nuestro grupo va a votar a favor desde luego defendiendo esos derechos para los parlamentarios autonómicos en el bien entendido que vamos a reclamar que los políticos no tengan ni más ni menos derechos que cualquier otro trabajador en

del estatuto del parlamentario que se remitió ya a las cortes generales y que corresponde volver a reiterar

a establecer privilegios para los políticos todo lo contrario para que tengamos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos no más pero tampoco menos y quiero anunciar que en relación con la representación que hay que mandar al congreso de los diputados hemos hecho una propuesta los principales grupos de esta cámara

por euskal herria bildu y miren gallastegui por el grupo socialista eskerrik asko pastor jauna

conste que mi intención era votar a favor de esta iniciativa y finalmente he votado equivocadamente en blanco

decirle que en relación con la propuesta que ha hecho el señor pastor estaríamos de acuerdo con la terna

ana otadui miren gallastegui y cambiaríamos el tercero por iñaki oyarzabal

bai maneiro jauna gracias presidenta únicamente para

apoyamos porque nos gusta más la terna propuesta